tráfico de influencias blanqueo prevaricación utilización indebida

en este contexto el medio de comunicación añadía que los compañeros de trabajo de de miguel no sabían no saben qué funciones laborales tiene

tanto usted como yo tenemos conceptos diferentes de lo que es trabajar el problema es que esta persona

que por lo que parece son ningunas con lo cual si eso es para usted trabajar y está blindado que esa persona pueda estar realizando no se sabe qué funciones dentro de una empresa que ni sus responsables inmediatos ni sus compañeros de trabajo saben a qué se dedica y que por ello sigue cobrando un sueldo es lo que aleja

la confianza de la ciudadanía en que los posibles casos de corrupción que se puedan dar dentro de las administraciones públicas luego no estén blindados con supuestos puestos de trabajo

en más de una ocasión y es que lo que parecería es que más que trabajar para la empresa

favores realizados durante años por aquello por lo que se le ha imputado y yo voy a creer que usted no lo sabía

déjeme creerlo y voy a creer que ustedes intentarán solucionar

llegar a preocuparse un tanto de cuáles son las funciones por qué se le ha vuelto a contratar y en este caso es y sobre todo

que existe si existe dentro de su partido para que esta persona pueda volver a la administración pública por la puerta de atrás cuando todavía sigue imputado

por haber realizado todo lo que anteriormente ya le he citado y que además existen grabaciones sobre ello con lo cual la veracidad de esas imputaciones parece que no se pone en duda esa es la pregunta que queríamos hacerle la pregunta y yo creo que la solución está en sus manos y en las de su partido y esperamos esas soluciones

lanaren zentzuaz concepto del trabajo y concepto de trabajar debatir yo con usted permítame que lo deje a un lado

lo que parece lo que parece lo que parece lo ha reiterado usted no sé en cuántas ocasiones lo que parece lo que dicen sus compañeros de trabajo

lehendakari sailburuok bueno no sé en realidad quién me va a responder a este pregunta

hemos conocido los últimos datos de paro en la comunidad autónoma vasca en febrero y hemos sido la comunidad autónoma que más ha crecido en términos porcentuales más uno punto siete con respecto a otras comunidades autónomas gaur egun

diciendo que tiene la esperanza que para el año dos mil veinte

descendido hasta los niveles del ocho por ciento y no voy a entrar a valorar los buenos deseos para el año dos mil veinte pero sí en lo que hoy podemos hacer en euskadi

ez dutelako bestelako diru sarrerarik y esto sitúa a lanbide en el centro de atención de todos nosotros podemos estar de acuerdo en que lanbide es el motor necesario para atender a los desempleados y también para gestionar el bienestar de todas esas personas que no tienen

su desempleo y no tienen otros ingresos y por lo tanto para no dejar a nadie abandonado a su suerte tenemos lanbide en euskadi y ahora mismo lanbide sufre paros

y durante unas horas lo cual está complicando muchísimo la gestión

de ingresos y en el origen de todos estos paros es malestar que existe entre los sindicatos por la rpt que se está gestionando en el gobierno orduan gure kezkak honako

señora mendia sabe usted perfectamente que el gobierno está buscando el acuerdo con los sindicatos

lo sabe en esta materia de forma permanente pero convendrá conmigo en que el acuerdo requiere la confluencia de voluntades no es solamente la voluntad del gobierno o del departamento de empleo políticas sociales

del acuerdo la voluntad negociadora del gobierno en todo caso ha quedado acreditada tanto en relación al número de puestos de trabajo de lanbide como a la propia tipología de los puestos a cubrir

demostrar algo con hechos se ha convocado la mesa sectorial de administración general en diez ocasiones para tratar cuestiones relacionadas con lanbide

diez meses diez reuniones acredita una inequívoca voluntad negociadora

el uno de enero del año dos mil once era de quinientos setenta y cinco personas y tras las negociaciones realizadas hoy la plantilla presupuestaria ochocientos cincuenta personas de quinientos setenta y cinco

hemos incrementado por lo tanto la plantilla estructural en un cuarenta y ocho por ciento en tres años

además como fruto de estas negociaciones se han realizado modificaciones en la tipología de los puestos de trabajo adaptando el modelo organizativo diseñado inicialmente por los responsables de lanbide y esto se ha hecho tras escuchar y aplicar las propuestas de los propios sindicatos señora mendia hemos negociado y seguimos negociando

y una vez aprobada los puestos de trabajo serán cubiertos de conformidad con la normativa vigente en función pública por lo tanto transparencia gardentasuna e igualdad berdintasuna

se hará de conformidad con el procedimiento para la provisión en comisión de servicios de puestos de trabajo de la administración general de la comunidad autónoma

lehendakari los datos que le aportaba al principio eran para enmarcar la importancia que tiene lanbide y el cristo que hay en la afección que puede tener en la rgi

mire le reconozco lo de la plantilla presupuestaria está en ochocientos cincuenta y además compete al gobierno establecer la estructura necesaria pero le ponía el marco

por lo tanto nos quedan muchos años por delante para gestionar muchos expedientes de rgi y muchos desempleados por lo tanto la plantilla es importante

y es otra de las cuestiones que usted sabe que está encima de la mesa así mismo también hay una injusticia bastante patente entre

y el nivel que se trata de poner a estos trabajadores que tienen una tarea muy específica porque usted supongo que conocerá que sufren presiones incluso en algunas ocasiones agresiones

por la bolsa específica pero también por esa tarea especial yo cuando estuve en tareas de gobierno creamos las plazas de zuzenean zuzenean también son funcionarios administrativos que tiene una tarea tan especial que es ser la cara del gobierno con los ciudadanos y esos son administrativos del gobierno y no tiene los niveles de los administrativos del gobierno tienen un diecinueve

porque son muy importantes y tendrán siempre nuestro apoyo para tratar de buscar el acuerdo con los sindicatos porque yo creo que que un directivo público muestre apoyo
a esos trabajadores que son la cara del gobierno eskerrik asko mendia andrea erantzuteko

lo hemos demostrado con hechos porque hoy lanbide insisto cuenta con doscientos setenta y cinco puestos de trabajo de carácter estructural más que hace tres años y me habla usted

cuentan con las garantías legales y se ajustan a los principios que antes he aludido transparencia e igualdad las propuestas de valoración que se hacen son técnicas

señora mendia transparencia e igualdad esta es nuestra voluntad la de negociar

a no ser que cuando usted habla de mantenimiento de empleo público usted está defendiendo en realidad el mantenimiento de personas concretas que no lo creo señora mendia

estoy seguro también de que llegaremos a un acuerdo para que lanbide pueda contar con su primera rpt

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari el pasado día veintiuno de febrero el llamado grupo de verificadores difundía un video sobre una supuesta entrega parcial

a nuestro juicio el video no suponía más que una pésima escenificación y un ejercicio de histrionismo político inaceptable eta actuaba en dicho video

ya que una vez finalizada su función teatral y en palabras de los propios verificadores lo recogió en una caja y se los llevó y décimos exiguo haciendo un ejercicio de generosidad

dieciséis kilos de explosivos cuando según las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

esta comparativa de cifras sirve señor lehendakari para que algunos realicen un ejercicio de realismo político

la verdadera dimensión de la esperpéntica escenificación realizada por eta y los llamados verificadores incluso alguien que ha volcado todos sus esfuerzos y energías en el mal llamado proceso de paz y que desde luego no es sospechoso de ser participe ni nuestro diagnóstico ni de nuestra estrategia en materia antiterrorista

ha expresado que la escenificación ha sido desafortunada y que ha restado credibilidad

verificadores por otro lado y que según sus propios testimonios fueron seleccionados por la propia eta para realizar dicha labor

es desconocido y que han participado en países con realidades muy ajenas a la nuestra el sábado día veintidós de febrero tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación

había bajado a madrid para dar su apoyo a los verificadores ante su declaración ante la audiencia nacional

pero queremos ofrecerle una segunda oportunidad para ver si usted ha sido capaz de realizar aunque sea en estos breves minutos un ejercicio de reflexión y reconoce el tremendo error que cometió por eso señor lehendakari

sigue considerando acertada su visita en apoyo de los llamados verificiadores

porque son personas a quienes conozco y con quienes trabajo desde hace años se encuentran en euskadi tratando de contribuir a un final ordenado de eta se entrevistan con los partidos políticos

se entrevistan también con los principales agentes económicos y sociales y se entrevistan también con los medios de comunicación o los representantes de los medios de comunicación

señora llanos no niegue usted la experiencia que

nunca en ningún lugar del mundo les había ocurrido nada similar ni parecido

preocupados no solo por el trabajo realizado en el pasado sino también por el que en el futuro podrían realizar

había declarado mi confianza en su labor en una misma declaración en la que reconocí que el paso escenificado por eta era pequeño y no suficiente y ante esta situación

insisto del ochenta y cinco por ciento de esta cámara también

señora llanos la comisión internacional de verificación lleva trabajando desde el año dos mil once lo sabe el gobierno español

lo que yo he hablado con él también en relación a la comisión internacional de verificación esta comisión ha asumido una labor que no está asumiendo el gobierno español y de esto si quiere podemos hablar en función de lo que sean sus futuras responsabilidades no lo digo yo

muchos representantes internacionales que han declarado que ningún gobierno en el mundo ha dicho no cuando una organización terrorista ha ofrecido deshacerse de sus armas

era poco menos que un acto de fe lo digo porque usted pronunció unas palabras que quizás por su suave acústica hayan pasado desapercibidas usted

como gesto histórico entiendo que la máxima autoridad institucional de este país no debe de dar ni dejarse seducir por un trailer de tan poca calidad cinematográfica

le hablo metafóricamente para que no se enfade pero no me acuse de frivolidad porque creo sinceramente que los actores de esta pantomima deberían de haberse esmerado mucho más

porque el montaje fue manifiestamente mejorable y lo preocupante señor lehendakari es que usted se empeña en darle la concha de oro a la mejor película tengo dudas sobre si su credulidad con respecto a eta consiste en un ejercicio de buena fe

políticamente el final de eta sea cual sea su intención señor lehendakari es que usted con este tipo de declaraciones le está haciendo el caldo gordo a eta utilizando un símil gastronómico está contribuyendo a cocinar el pil pil político

que si el principal ingrediente es eta le puedo asegurar que el resultado final de la salsa no tendrá ningún regusto democrático

verle en la audiencia nacional acompañando a las víctimas en los múltiples juicios que contra los etarras ha habido pero no

internacionales nosotros tenemos el copyright de los verificadores que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deje de obnubilarse con la idea de pasar a la historia por ser el lehendakari que consiguió traer la paz a euskadi y trabaje desde la lealtad con el gobierno de españa para que juntos

legebiltzarburu andrea señora llanos me apela

puestos a rectificar por qué no rectifica usted me denuncia que yo califique de un gesto histórico mire

trabajo de los verificadores internacionales constatar

de las armas en atentados cometidos sino también de la amenaza del chantaje de la extorsión

de eta pequeño no suficiente de voluntad de desarme con una escenificación ridícula si se quiere sí en la cantidad pero muy importante en lo que es lo cualitativo de que es la primera vez

que muestra su voluntad de desarme de manera gráfica señora llanos le quiero recordar algo que usted elude y es que las personas de la comisión internacional de verificación fueron llamadas a declarar acudieron declararon y salieron en libertad

ha utilizado usted las mismas expresiones pantomima y ha utilizado también a las víctimas

ha declarado algo evidente para todo el mundo excepto para ustedes en un proceso de paz tienen que participar los gobiernos y es lo que estoy intentando como lehendakari que el gobierno español también participe el gobierno vasco

quiero seguir trabajando con las formaciones políticas en conseguir paz y convivencia eskerrik asko lehendakari jauna

presento esta interpelación en nombre del grupo popular referente a los propósitos que tiene el gobierno para el impulso y la promoción de la agricultura ecológica en nuestra comunidad autónoma

productiva económica y empresarial que tiene por delante un elevado potencial de crecimiento el sector agroalimentario ecológico español ha experimentado

hasta situarse hoy como el primer estado miembro de la unión europea en superficie dedicada a esta forma de producir y en los primeros puestos a nivel mundial el quinto concretamente hay que recordar que el primer reglamento europeo que regula esta producción data del año

hoy la producción ecológica se encuentra regulada por el reglamento ochocientos treinta y siete barra dos mil siete sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos en el país vasco en el año dos mil doce la superficie total de agricultura ecológica

de las cuales mil quinientos sesenta y cuatro están calificadas cuatrocientos veintinueve están calificadas en conversión

están en primer año de prácticas ocupamos el puesto diecisiete entre las comunidades autónomas en superficie de agricultura ecológica de españa

en el año dos mil doce es de trescientos cincuenta y tres un descenso de cuarenta y dos operadores de los cuales veinte son productores agrarios

al viñedo se dedican quinientos noventa y siete al cereal se dedican ciento treinta y cuatro a frutales ciento setenta y cuatro

existe una diferencia importante entre la evolución de la producción de la agricultura ecológica en otras comunidades autónomas

siempre hemos ocupado los puestos de cola el día veintiocho de febrero comparecieron en esta cámara representantes del consejo vasco de agricultura y alimentación ecológica y pusieron de manifiesto algunas carencias que lastran el crecimiento de este sector y futuros desarrollos

permanentes para la agrupación y acondicionamiento del producto para la comercialización también manifestaban ausencia de infraestructuras necesarias para realizar transformación

hacia una profesionalización de sus estructuras productivas esto se ve claramente

en volumen de producción calidad y aspecto los productores detectan y manifiestan la necesidad de avanzar en medidas que generen mayor valor añadido

busca este consumidor una alimentación más saludable cercana y de alta calidad los estudios realizados a nivel nacional sobre el hábito de los consumidores indican que la demanda interna de los productos ecológicos se mantiene y en algunos casos aumenta ligeramente

es un dato positivo teniendo en cuenta la situación económica general en nuestra comunidad autónoma según se nos informó la demanda supera la oferta en varios productos si nos fijamos en la producción de cereales las producciones no llegan ni de lejos para cubrir la demanda tanto para alimentación animal por ejemplo para piensos

y otros procesos ligados con este tipo de producción podemos decir que la producción ecológica es un sector con perspectiva de futuro muy positiva

es una estrecha colaboración y coordinación interinstitucional para poder coordinar todos los eslabones de la cadena de producción ecológica desde la producción hasta el consumidor

también nos manifestaban quejas de otros sectores por ejemplo el sector productor de carne sobre las dificultades

cuál debe ser su modelo de comercialización si debe

de comercialización con menor valor añadido qué pasa con la transformación esta misma pregunta también se hacen desde el subsector

necesitan y así nos lo decían estructuras para transformar o elaborar en determinados periodos

como picos de producción muy concretos dispersión de las producciones está claro que en nuestra comunidad autónoma existen

administraciones que tienen interés en promocionar la agricultura

como también en varios ayuntamientos del país vasco desde el grupo popular señora consejera y me consta que también desde el sector de producción ecológica observamos la ausencia de un eje vertebrador donde apoyar las actuaciones que son necesarias para el desarrollo

nos referimos a tipos o actuaciones de tipo técnico asesoramiento formación investigación actuaciones de tipo organizativo centrales de compra y venta localización de semillas de variedades locales que tienen una mejor producción en nuestra tierra

demanda compleja de atender pero solicitada por todos los subsectores actuaciones para la mejora de la comercialización

de la producción ecológica desde el grupo popular entendemos que las oportunidades y fortalezas del sector de la producción ecológica están muy claras

y debemos de saber atender y colaborar y resolver estas demandas con perspectivas de futuro por lo tanto señora consejera

para apoyar la promoción y comercialización de la producción ecológica

señora lópez de ocariz no puedo estar más de acuerdo en algunos de los datos que nos ha facilitado

existe un reglamento del año dos mil siete que regula la producción y etiquetado de todos los productos ecológicos no solo agrarios sino también ganaderos como usted hacía referencia

a los que hemos llegado en la comunidad autónoma no son los mejores son claramente mejorables además el mismo reglamento y quiero hacer hincapié en ello reconoce un papel social

aportando por un lado sí productos ecológicos pero también bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente y a la mejora del bienestar animal y del desarrollo rural por el que me consta que también su grupo está preocupado si nos comparamos con la unión europea es cierto que si ponemos grandes datos al menos allí la agricultura ecológica llega a un cuatro por ciento en el estado español

de esos parámetros a los que como media nos suele gustar llegar en todos los ámbitos y también en este sin embargo sí hay algún dato que nos hace ser un poco más optimistas y es que

a pesar de la crisis que también a afectado al sector agrario hemos mejorado la producción en productos agrarios y productos ganaderos de tipo ecológico si nos fijamos en la trayectoria de dos mil a dos mil trece

en cuanto a superficie total inscrita también hemos crecido aunque existen claras diferencias entre territorios también pero ello no obsta para que emprender una actuación concreta para llegar como mínimo a esa media europea no voy a hablar casi de la cabaña ganadera porque realmente es prácticamente inexistente no llegamos

por ciento respecto de todo el total ya desde el dos mil doce se incluyó un programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis con el objetivo de

e iniciar el fomento de la producción ecológica en la actualidad desde el departamento estamos elaborando un plan estratégico de agricultura ecológica de euskadi de la mano

para poder hacer frente a esta situación y ponernos en los ámbitos en los números

queremos trabajar y estamos trabajando en la redacción de ese programa con el resto de administraciones con las diputaciones forales y el resto de administraciones territoriales con otros agentes sectoriales en establecer un modelo de producción que tiene un marcado carácter prioritario en los objetivos

llevar a cabo son las que a continuación voy a detallar por una parte apoyar al propio consejo de agricultura ecológica en todas sus funciones porque creemos que es un ámbito en el que se aglutina todos los productores o la mayoría de ellos y puede servir además de referencia para los que se quieren incorporar la facilitación a lo operadores ecológicos a través de una subvención

inicialmente una medida escasa pero que contribuye a que todos se encuentren dentro de un mismo consejo impulsamos la formación y transferencia de información que existe en todo lo del ámbito de agricultura y ganadería ecológica

de priorizar todas las iniciativas que trasladen experiencias de producción ecológica directamente a las explotaciones

que se pretenden poner en marcha atendiendo de una forma especial a través de un erasmus agrario que observe otras experiencias y que las pueda atraer a euskadi en este mismo sentido además se considera determinante por todos los agentes que están trabajando en este plan reforzar la estructura de prestación y utilización de servicios de asesoramiento y formación

comentaba además creo que usted misma que necesitamos establecer ayudas a esos agricultores a esas agrupaciones que participen por primera vez en la agricultura ecológica

además vamos a tratar de promocionar ese distintivo de una forma específica de tal forma que se cree claramente una marca de agricultura ecológica que esté

y que sea atractiva para todos los consumidores en lo relativo a apoyo a inversiones también en activos físicos en este tipo de explotaciones agrarias

iniciativas que impulsen diferentes circuitos de comercializaciónn tanto los de ciclo corto como los más amplios

también buscaremos ayudas directas que puedan percibir los productores de productos ecológicos para compensar adecuadamente que realmente se trata de una producción diferenciada

de tal forma que podamos contribuir a que se produzca ese crecimiento

decisiva se enmarca en una cooperación en especial con todas aquellas actividades y todos aquellos agentes que trabajen en aspectos relativos a la innovación a través de apoyo de iniciativas tales como desarrollos de proyectos piloto cooperación con otros agentes tanto locales como de otros ámbitos del estado español como internacionales organizando procesos de trabajo en común incluso compartiendo instalaciones concretas que sean de coste elevado

tratando de implementar o desarrollar cadenas de distribución completas

nivel elevado y buscando que las actividades de promoción tanto en el contexto local como

el mayor rendimiento posible sí es cierto insisto todos los circuitos de comercialización de producción inicialmente comercialización transformación deben ser mejorados deben ser atendidos de forma especial no solamente

buscando un nuevo modelo que sea realmente competitivo y que nos permita también atender este tipo de demanda para toda la ciudadanía que así lo requiera estos son nuestros propósitos el trabajo que estamos realizando para elaborar el plan estratégico de la mano del sector y sobre todo de la mano del consejo y en cuanto tengamos un primer borrador desde luego

y que nos permita tener un desarrollo futuro garantizado eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea jarraian lópez de ocariz andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta señora consejera efectivamente para el grupo popular el sector de la producción ecológica es muy importante ayer mismo el ministro presentaba la estrategia de agricultura ecológica

hace pocos días presentaba el diputado foral de álava de agricultura también un plan estratégico para álava por lo tanto para nosotros es un sector

vasco es pequeño en volumen pero grande en cuanto a importancia estratégica porque es una alternativa a las producciones convencionales y creo que eso es importante con necesidades aparentemente muy básicas pero a la vez complejas de resolver

para resolverlas debe pasar por un apoyo conjunto y coordinado por todas las administraciones competentes y además ligado con el sector

apoyar la evolución de la consolidación de la producción ecológica fomentar el consumo mejorar la comercialización de productos ecológicos también la transformación y reforzar la vertebración del sector el gobierno

por lo tanto pues estamos de acuerdo en que se impulsen acciones para conseguir los objetivos que le decía anteriormente hay una cosa de su departamento señora consejera que creo

hacer visible la agricultura ecológica en sus estadísticas hoy no existe creemos que en sus datos estadísticos de producción del país vasco debe tener un apartado la producción ecológica del mismo nivel y de la misma importancia que el resto de producciones por lo tanto yo le animo a que trabaje en este ámbito y haga visible la agricultura ecológica

en cuanto a divulgación al consumidor y al ciudadano

y luego nos hablaba de una serie de acciones que nos parecen importantes como le decía en mi anterior intervención pero creo que nos tenemos que

cuando hacemos los planes estratégicos a evaluar y poner unos

tiene el efecto o conseguimos intentamos conseguir el objetivo que estamos buscando por lo tanto yo le animo a que además el plan estratégico que están haciendo

y luego que efectivamente el plan de desarrollo rural tenga un eje especifico para la agricultura ecológica se puede hacer creo que es importante ya le hemos dicho en anteriores ocasiones que nos parece que el pdrs debe tener unas líneas

específicas para apoyar a los productores los productores son el eje de toda la cadena por lo tanto es fundamental reforzar el sector productor y en este caso el sector productor de agricultura ecológica y nos parece importante que se marque una línea específica para la agricultura ecológica estos son los aspectos generales que nos parece que la agricultura ecológica necesita en este momento como le decía

estratégica por lo tanto tenemos mucho trabajo por delante y me parece interesante que trabajemos todos de manera coordinada

no puedo estar más de acuerdo en lo que decía efectivamente todas las administraciones competentes tenemos que tenerlo como eje estratégico en eso estamos trabajando y nuestra pretensión desde luego es que este plan lleve el acuerdo de todos

avanzar en cuota que es importante también ello redundará en la mejora de la producción seguro y además en la creación de empleo por qué no también

todos estamos de acuerdo en asentar población en todo el ámbito rural también ahí va a contribuir

estoy de acuerdo por tanto haremos el esfuerzo correspondiente para que se encuentre perfectamente dentro de nuestros análisis

tan importante tan crucial creemos que aquí tiene que ser un eje de los estratégicos dentro de lo que vamos a realizar

porque creemos que lo tenemos que hacer porque creemos que es un eje importante y porque además va a redundar en la mejora de otros muchos aspectos y no voy a repetir lo que comentaba

permítame la palabra maniática con el tema y me gusta evaluar todo lo que realizamos

y su metodología de mejora si no se van cumpliendo los objetivos que nos pongamos de forma anual no tenga

va a ser y también comentarles que a pesar de que ya lo he dicho en otras ocasiones en la cámara estamos trabajando para firmar un convenio a la mayor brevedad esperamos que el próximo mes también con la generalitat de cataluña para tratar de fomentar este tipo de agricultura mejorar todas nuestras actuaciones aprender de sus

el convenio tendrá otro tipo de actuaciones pero sobre todo queremos observar su buena práctica en agricultura ecológica porque creemos que tenemos mucho que aprender
como bien decía tenemos mucho trabajo por delante y espero que todas las administraciones colaboremos para sacar adelante este objetivo eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

eta gure ustez gehiegikeri berri baten aurrean egongo ginateke se apunta a que para la gran mayoría de puestos y categorías se obligará a tener el nivel ce uno mientras que periodistas y lingüistas tendrán que tener

los que no tengan esos perfiles asignados no podrán volver a optar a la promoción interna y la liberación para estudiar euskera se limitará a los mayores de cuarenta y cinco años

decenas de puestos de trabajo que en este momento están ocupados por periodistas con una muy dilatada y contrastada trayectoria profesional que no podrán ni siquiera concurrir a ella porque no cumplirán el requisito de perfil lingüístico lo que está provocando

onartu ziren así pues como puede usted comprobar el plan de euskera de e i te be para el periodo dos mil trece dos mil dieciséis

en el preciso momento en el que se está preparando una ope para radio euskadi como usted indica sino que se trata de una decisión adoptada en dos mil once atendiendo a tres compromisos

cumplir con la legislación aplicable en materia lingüística y concretamente con los decretos del gobierno vasco para la normalización lingüística en la administración pública por otro lado cumplir con el compromiso adoptado en el convenio colectivo de etb en dos mil ocho como he mencionado y por último cumplir con el propósito establecido en el tercer plan estratégico de adoptar una perspectiva interna de carácter empresarial

como usted bien sabe estos procesos suelen ser harto prolongados en el tiempo y en este caso concreto

marzo de dos mil once se alcanza un acuerdo sobre la metodología noviembre de dos mil once

así como la primera fase de diagnóstico marzo de dos mil doce se aborda la segunda fase del diagnóstico

se consigue el acuerdo y firma de la comisión paritaria sobre las líneas estratégicas

inmediatamente después se procede a su presentación al equipo directivo enero de dos mil trece

se materializa la firma del acuerdo por parte de la comisión paritaria sobre el plan de euskara

iniciado en la anterior legislatura en el que a la actual dirección general le ha correspondido la función de asumir el plan e implantarlo en todo caso

avalamos la decisión adoptada en dos mil once así como el resultado del proceso mencionado

en distintos ámbitos en los que la normalización lingüística se refiere

lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer horregatik eitb euskaldunez osatutako audientziaren bila arituko da aktualitateari

y es ciertamente curioso y es un hecho que a ustedes cualquier cosa que se haga

le parece insuficiente y siempre quieren más y se olvidan permanentemente de los derechos de decenas y decenas en este caso de trabajadores de la propia e i te be

ustedes no tienen límite en este asunto hablan

porque e i te be debe cumplir el compromiso adquirido a favor del euskera y de la cultura vasca hasta ahora no ha cumplido ese compromiso

hasta ahora no lo ha cumplido habla usted de cumplir la legislación aplicable hasta ahora no se ha cumplido esa legislación hace falta más y más

cuándo va a acabar esto señora consejera no hay límites piensan pasar por encima de todos los derechos perjudicando en este caso a decenas de trabajadores a nosotros nos parece una nueva de tuerca en las obsesiones lingüísticas las plantee el gobierno socialista o las plantee el gobierno del partido nacionalista vasco que por cierto son ustedes

avalan ya digo nivel ce uno para todas las categorías nivel ce dos para periodistas y lingüistas nivel be dos para los puestos que no son centrales en e i te be los trabajadores que entraron por oposición se les respetará el nivel de euskera que acreditaron al entrar

interna sino coincide su nivel con el exigido en este plan de euskera si son elegidos para cargos de confianza y tienen más de cuarenta y cinco años estarán

el perfil lingüístico a los becarios y estudiantes en prácticas se les exige el perfil para el puesto que son contratados en las oposiciones será necesario acreditar el perfil el proceso de selección en relación a los contratos exteriores cuando el servicio haya de ofrecerse en las sedes de e i te be se les exigirá también por contrato que sus trabajadores el perfil lingüístico se introduce la figura del tutor lingüístico y se organizarán parejas tutor pupilo para estar juntos a la hora del café se establece un protocolo de bienvenida para los nuevos para darles a conocer que en e i te be se ha apostado por el euskera

o al menos prioridad en euskera hacia el exterior la primera relación se hará en euskera los productos exclusivos de e i te be se ofrecerán solo

una larga batería de medidas que suponen una nueva vuelta de tuerca en las obsesiones lingüísticas de algunos pretenden que en dos mil dieciséis el plan se cumpla en el noventa por ciento curiosamente con los menos exigentes son con la dirección

de cumplimiento mientras que para el personal de plantilla becarios y responsables de áreas se fija como objetivo el cien por ciento en nuestra opinión un cúmulo

y de excesos una nueva vuelta de tuerca en las obsesiones lingüísticas del partido nacionalista vasco que perjudicará a decenas de trabajadores esto

al control político del ente por parte del partido nacionalista vasco se suma este nuevo abuso absolutamente inaceptable y queda encima según nos dice usted un largo camino por recorrer cuándo vamos a llegar

cuál es el límite señora consejera cuál es el límite

se realiza o se ha realizado de modo natural y de modo tranquilo en absoluto se ha hecho de modo natural y de modo tranquilo se ha hecho a base de imposiciones

a base de excesos yo lo que le pido con toda naturalidad no nos cansamos ya lo ve le pedimos que abandonen sus obsesiones lingüísticas respeten la libertad de la gente

exijan euskera a los trabajadores cuando sea necesario para realizar el trabajo que les corresponde cuando sea necesario deberán acreditar perfil lingüístico cuando sea necesario deberán saber euskera pero en absoluto puede ser considerado necesario el euskera para todos los trabajadores de e i te be

esto es un exceso y un abuso creo que esto lo entiende cualquier ciudadano donde sea necesario sí pero donde no sea necesario evidentemente no

etb se ha fijado en su plan estratégico dos mil trece dos mil dieciséis contribuir a dar visibilidad a esta nueva realidad

ya que hay una divergencia entre conocimiento y uso por ello e i te be se ha propuesto ser un agente activo

dando respuesta a la demanda de la sociedad actual pero la apuesta por el euskera no debe entenderse como un escoramiento ideológico

el euskera es patrimonio de todos los vascos y vascas y así lo demuestra la progresiva utilización de nuestra lengua en todos los ámbitos por ello lo medios cuya lengua vehicular es el castellano

de esta forma se visualiza positivamente la normalización y generalización de la presencia de personas euskaldunes

la crisis económica actual está acelerando intensamente la necesidad de sinergias en el trabajo para operar de manera eficiente isiltasuna mesedez este proceso de optimización es irreversible

y en todo tipo de empresas en estas circunstancias e i te be debe adaptarse a la nueva situación tomando como referencia las tendencias de los grupos públicos de máximo prestigio informativo

producir contenidos para los diversos medios y canales y ese es el futuro que nos planteamos para e i te be

y del plan de euskera recogido en él planes que contribuirán a lograr las sinergias que demanda el periodismo del futuro eskerrik asko uriarte andrea

la pregunta es muy sencilla el parlamento vasco ha aprobado que el gobierno vasco financie con

hay ochocientos setenta y ocho alumnos en vitoria que me reclaman una respuesta y he venido a preguntarle señora consejera

ni en ocasiones posteriores es muy importante para ellos y es muy importante también

me sorprende me está preguntado como alcalde y no sé si era como parlamentario como me tenía que preguntar pero lo que sí tenemos claro es que la enseñanza musical ha experimentado un importante grado de avance en las últimas décadas y gracias a esta evolución la escuelas musicales desde su creación en mil novecientos noventa y dos

social formativa y cultural sin embargo existen algunas deficiencias

y no estamos hablando posteriormente si estamos hablando del pasado finantziatzioaz ari naiz nire ustez begi bistako arazo bat dago musika eskolen

vez hay un compromiso de financiación

los presupuestos del gobierno vasco no apuntan en esa dirección como alcalde

a usted al lehendakari y a cualquier consejero como parlamentario también además debo trasladar una respuesta a los ochocientos setenta y ocho alumnos

por el futuro de esa escuela la financiación es un asunto muy relevante y muy importante porque la aportación del gobierno vasco va siendo inferior año tras año soy consciente en primer lugar también esto se lo he trasladado a usted y al propio lehendakari de las dificultades y a otros consejeros de su gobierno

el gobierno cualquier gobierno sea este de cualquier nivel de la administración para financiar los servicios mi pregunta es en el mejor de los tonos cuál es la tendencia

nos diga si el objetivo es cumplir ese

y cuándo porque esa es una respuesta que los usuarios que los alumnos entienden cualquier otra cosa más ambigua no se entiende no la voy a entender yo no la va a entender nadie

le vuelvo a decir me tiene de su lado como parlamentario como alcalde como ciudadano como quiera para colaborar con ustedes porque para eso estoy para eso estamos pero también las respuestas tienen que ser serias tienen que ser contundentes y tienen que ser firmes

es así de evidente es así de claro señora consejera muchas gracias

este gobierno está trabajando de la mano de las escuelas de música y estamos haciendo un diagnóstico

también figura este compromiso y desde luego el gobierno actúa con responsabilidad y rigor primero estamos haciendo un estudio estamos elaborando un plan de acción

saben ustedes en estos momentos la preocupante situación económica en la que nos encontramos y estamos trabajando en ello pero seriamente con rigor

todas no una todas eskerrik asko

y agresiones que sufren los profesionales de la salud en el desempeño de sus funciones desde los simples malos modos hasta lo que puede ser una agresión física o verbal además de una necesidad es una obligación que compete a todos los poderes públicos

multidimensional del problema a partir de un principio básico ante las agresiones tolerancia cero

como ante cualquier otro tipo de violencia el ejercicio

tiene un fuerte componente de servicio deseado por toda la sociedad en el que la confianza constituye un elemento fundamental por ello la erupción de la violencia en los escenarios sanitarios en cualquiera de sus manifestaciones

agredidos afecta también de forma sustancial a la actividad sanitaria uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar

y consumo del parlamento vasco para explicar las agresiones de las que son objeto en el ejercicio de su trabajo profesional

en concreto ellos como personal de enfermería y auxiliar de enfermería en dicha comparecencia destacaron entre otras cuestiones los riesgos de padecer agresiones por el especial contacto y trato con los pacientes y la desprotección existente y la que sienten ellos en primera persona

en cuanto al registro de agresiones hicieron referencia que las agresiones en el ámbito sanitario es el riesgo laboral que menos se declara por la dificultad que acarrea el tener que interponer denuncias de forma personal con nombres y apellidos hecho que lleva

no se recoja una foto real de las agresiones que se producen según los comparecientes se recoge

en este ámbito en cuanto al observatorio que aquí se denomina en esta comunidad autónoma en la comunidad autónoma del país vasco se denomina comisión técnica de agresiones

y que en ese sentido euskadi no tiene un observatorio en sentido estricto

agredida y pusieron algún ejemplo concreto en relación a esta cuestión respecto al asesoramiento jurídico existe una guía tal y como nos señalaron pero dijeron que es prácticamente desconocida y nuevamente apuntaron el handicap de tener que ir personalmente a interponer la denuncia que lleva a desistir de

en relación a la participación de los profesionales se planteaba la dificultad de que no tengan foros específicos de participación en cuanto a las campañas informativas señalaron que no se conocen respecto a las medidas organizativas pusieron de manifiesto

específico a tenor de lo puesto de manifiesto en esta comparecencia así como otros datos que constan también en el último informe del observatorio de agresiones de la organización médica colegial entre otras las agresiones aumentaron los últimos años y es una realidad que no se puede obviar

específicas en este sentido para reducir las agresiones a los profesionales sanitarios así como para paliar sus efectos además del apoyo psicológico en el ámbito jurídico son necesarias medidas

a los profesionales de una seguridad y formación necesaria para minimizar las posibles agresiones que puedan sufriren sus centros de trabajo el grupo de trabajo de agresiones a profesionales del sistema nacional de salud constituido en el ministerio de sanidad servicios sociales igualdad ha elaborado

concretas hemos conocido recientemente porque es de fecha de seis de febrero ante la problemática de las agresiones del personal sanitario en este informe bastante exhaustivo

entre otros aspectos y se abordan las siguientes cuestiones un enfoque integral y participativo

la cultura de la tolerancia cero a la que hacía referencia anteriormente la importancia de la investigación de las causas de las agresiones la identificación de los puntos críticos

la puesta en marcha del sistema de información de agresiones del sistema nacional de salud la determinación del conjunto de datos básicos

de recomendaciones dirigidas a los profesionales del sistema nacional de salud la tendencia a la homogeneización de los registros de agresiones de los servicios de salud

el apoyo y asesoramiento a los profesionales afectados la importancia de las medidas destinadas a los usuarios del sistema nacional de salud y también se hablaba y se habla de un régimen sancionador así como de una evaluación periódica de la eficacia de las medidas que se puedan adoptar estrategias para incrementar la eficacia de dichas medidas por lo tanto es un informe

recomendaciones y medidas concretas por todo ello ante la constancia de que existe una preocupación en el profesional sanitario de la comunidad autónoma

en este caso del personal de enfermería preguntamos concretamente

sí es propósito del departamento de salud del gobierno vasco incrementar las medidas existentes para reducir las agresiones que sufre el personal sanitario que trabaja en la sanidad pública vasca

paliar sus efectos y prevenir posibles incidentes en el futuro besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

de explicar en esta cámara las medidas que ofrecemos en osakidetza para proteger a nuestros profesionales de circunstancias violentas

y que realmente son difíciles de evitar en su totalidad sin duda su requerimiento

que compartimos todos como sabrán nosotros también hemos solicitado la comparecencia

porque a veces comparecencias parciales solo muestran una cara del problema quisiéramos matizar algunos de los datos

poniendo de relieve el trabajo que osakidetza hace para proteger a sus trabajadores por lo tanto

que me dé la oportunidad de informarles del trabajo que los diferentes ejecutivos han realizado desde el año dos mil tres más de diez años y que tenemos pensado ampliar y mejorar con el único objetivo de proteger a los profesionales que trabajan en osakidetza dicho esto quisiera también poner en valor nuevamente el importante trabajo que todo el personal de osakidetza médicos

auxiliares celadores personal administrativo etcétera realizan a diario así mismo me parece oportuno agradecer también a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos el respeto y el trato con que habitualmente se nos dispensa porque señorías venimos a hablar de excepciones que desgraciadamente

erakusten duen errespetua muchos de ustedes me habrán oído agradecer más de una vez públicamente el trabajo

y lo pongo en valor cada vez que tengo oportunidad soy parte de ellos

el nuestro no sería hoy en día el sistema sanitario del que la sociedad

nuestros profesionales son habitualmente muy vocacionales y aunque su trabajo es gratificante es también duro enfrentarse a la pérdida de salud a la enfermedad

y de gran tensión por qué no decirlo al contacto diario con todo tipo de personas y situaciones en urgencias en salud mental en unidades de cuidados intensivos en la misma atención primaria resulta a veces difícil dedicarse al servicio sanitario en su más amplia concepción señorías puede ser duro sin duda otras muchas profesiones también lo son pero nuestro deber como responsables del departamento de salud

y sobre todo poner los medios para evitar que tengan que sufrir circunstancias de violencia ajenas a su quehacer somos conscientes del problema

y del departamento de salud también para ponderar el problema

hay que poner en la balanza que somos un servicio universal atendemos a toda la población y realizamos anualmente casi dieciséis millónes de consultas

hospitalarias incluyendo ingresos involuntarios en hospitales psiquiátricos de pacientes muy agitados etcétera es decir

personas de todo tipo así las posibilidades de que se den circunstancias desagradables y lamentables es directamente proporcional al nivel de actividad y por supuesto

y nuestros pacientes son fiel reflejo de esta sociedad plural por esta razón ya en el año dos mil tres

y se convirtió en una organización pionera en el abordaje de situaciones violentas contra sus profesionales

a los trabajadores y desde entonces hemos seguido avanzando guretzat profesionalen segurtasuna lehentasun bat da urteak daramatzagu

aunque ha mejorado puesto que se ha revisado en los años dos mil seis y dos mil nueve el protocolo incluye

y cuantificación de situaciones de violencia garantiza su consideración laboral como accidentes o incidentes de trabajo y permite la adopción de las medidas correctoras pertinentes para evitar nuevos episodios de violencia además el protocolo establece la forma en que los trabajadores reciben la ayuda y orientación

respecto a las acciones judiciales a emprender el protocolo también da respaldo a una comisión técnica de situaciones de violencia que existe con la finalidad de valorar las agresiones analizar las pautas de actuación seguidas por osakidetza y representar a los trabajadores agredidos

un manual informativo corporativo que está disponible en todas las organizaciones de servicios en todas las unidades de prevención en las carpetas rojas de prevención ubicadas en todos los centros de osakidetza y también en la propia intranet

también se explica en todas las acciones de formación de prevención de riesgos laborales también osakidetza fue pionera en el año dos mil ocho

firmamos una declaración conjunta de la entonces dirección de osakidetza

contra las agresiones a los trabajadores declaración pionera en su momento y que el ministerio ha utilizado posteriormente

también hemos impulsado otras medidas también importantes destacaré algunas

del botón antipánico en los ordenadores de un importante número de puestos concretos de las organizaciones consideradas de alto riesgo se han realizado cambios estructurales en los servicios críticos tales como urgencias consultas

etcétera se han estudiado y realizado cambios en la disposición del mobiliario en instalaciones de riesgo se ha ofrecido en cada organización formación específica

de violencia algunas de nuestras organizaciones las que más situaciones han tenido tienen comisiones específicas para analizar las situaciones de violencia

con los vigilantes de seguridad de los hospitales y algunos sitios también con la policía local

osakidetza lleva tiempo trabajando en este tema hay una participación muy activa de la subdirección

y se asume de forma directa la información el asesoramiento el acompañamiento y la defensa jurídica de los trabajadores

pero la denuncia forzosamente tiene que ser personal en dos mil trece se ha prestado asesoramiento y defensa jurídica a veintiocho trabajadores de los cuales

y otros catorce han sido judicializados siete

condenatoria cuatro a lo largo del proceso los trabajadores han renunciado a seguir el procedimiento y tres están sin finalizar

hecho público y que fue el que manejo el sindicato de enfermería no se constata un incremento de las mismas en los últimos años de forma que en dos mil trece

actos lo cual supone una reducción importante respecto a dos mil doce en que se contabilizaron cuatrocientos setenta y dos y son prácticamente las misma que las registradas en dos mil once

la disminución observada el número de accidentes graves que son ciento seis

a ciento veinte en los cinco años anteriores también tengan presente la preocupación de osakidetza sus trabajadores y sus representantes legales por este problema y el trabajo realizado al respecto

su preocupación por la situación a la mayoría de la ciudadanía su respeto

desde el año dos mil tres para proteger a sus profesionales y hemos colaborado de forma muy activa en el protocolo que ha presentado el ministerio
año cualquier iniciativa en este sentido que el parlamento y sus señorías puedan ofrecernos será bienvenida eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

señor consejero le agradezco las explicaciones y sobre todo que nos anuncie aquí que vamos a tener una comparecencia específica del director de recursos humanos si no le he entendido mal

podremos abordar este tema sin las limitaciones

las interpelaciones y con más tranquilidad y seguramente con más profundidad en la propia comisión de salud y consumo sí nosotros también queremos hacer un reconocimiento a la labor que realiza los profesionales sanitarios pero aunque sea algo excepcional o si no fue tan excepcional como usted ha señalado aquí

de salud no puede obviar y yo de hecho creo que no

y sí que creo también del mismo modo que el propio consejero estaba diciendo que en algunas materias

hemos podido ser pioneros sí que creo también

algunas comunidades autónomas en los últimos tiempos estén en mejor situación que nosotros

concretos en relación a las agresiones al personal

ese avance y nosotros por lo tanto ahí sí que pedimos una reflexión

mejorados el tema del registro el tema de la guía porque está muy bien señor consejero que haya una guía pero si no se desconoce es papel mojado por lo tanto ahí habrá que hacer alguna acción concreta

se nos dijo aquí que profesionales y con algún acontecimiento recientemente acaecido se nos decía pues que se habían sentido desprotegidos en este sentido y que no habían recibido una llamada posteriormente a la agresión yo creo que estas

algo es evidente es que algunas de las agresiones por desgracia dejan secuelas algunas físicas y otras psicológicas y por lo tanto

descuidar el tema de la prevención y el tema de la formación es fundamental yo creo que

hincapié efectivamente el dato usted lo ha dado cuatrocientos tres personas registradas pero sin duda

tal y como está ahora arbritado el sistema tiene que obviamente ser de forma personal y uno tiene que a interponerla pero sí que

no quita para que lleguemos a la conclusión de que por esa circunstancia concreta

las agresiones que se puedan producir y por lo tanto el sistema no las computa como tales en definitiva señor consejero también la interpelación la consideramos absolutamente oportuna al hilo de las conclusiones del grupo de trabajo de agresiones a profesionales del sistema nacional de salud de fecha de seis de febrero

como tenemos una comparecencia con el director de recursos humanos también les preguntaremos específicamente si alguna de las medidas concretas aquí las ven oportunas se plantean también adoptar nuevas medidas es decir

pero creo sinceramente señor consejero que no

pioneros pero no nos podemos dormir porque es una realidad que esta ahí y no la podemos obviar

bueno comparto con usted y probablemente con todas las personas de la cámara y nos preocupa enormemente con que hubiera una sola situación de violencia a alguien que está

nos preocuparía realmente la comparencia del director de recursos humanos estaba solicitada la misma semana a continuación de que supimos

es público lo tiene usted a su disposición si es que lo quiere antes de que comparezca el director de recursos humanos y nosotros hemos participado activamente con nuestro conocimiento en la guía del ministerio pero tenga usted presente que la guía del ministerio se ha publicado este mes por lo cual difícilmente nosotros podemos hablar de las

los años precedentes sobre una guía que estaba en febrero como ya he explicado en mi primera intervención osakidetza cuenta desde año dos mil tres con numerosas medidas para prevenir las situaciones de riesgo

y en eso creo que vamos de la mano con las organizaciones sindicales con las asociaciones de pacientes y con los trabajadores y aunque como también he señalado en los últimos años

no han aumentado llevamos meses también trabajando en ampliar y mejorar nuestros campos de acción

estas situaciones no son lo habitual pero son muy importantes cuando se producen y necesitamos darle una solución y sin duda es una prioridad para osakidetza y para el departamento de salud que los profesionales cuando les ocurre

se sientan atendidos y podamos hacer por ellos todo lo posible y sobre todo prevenir en la medida que esté en nuestra mano que se produzcan la inmensa mayoría

por eso a lo largo de los próximos meses tenemos previstos seguir trabajando las acciones de protección

anteriormente y queremos poner en marcha también otra nueva serie de iniciativas en este sentido siendo las agresiones un posible factor de riesgo psicosocial de los puestos de trabajo de osakidetza que usted lo ha mencionado vamos a incluir su valoración

en determinados servicios como las urgencias o especialmente los servicios de salud mental vamos a incidir en los protocolos de acogida de nuevos trabajadores y trabajadoras

a determinadas actitudes de pacientes para evitar estados de ánimo violentos hemos ya

un nuevo cuestionario a los trabajadores y trabajadoras sobre situaciones de violencia que tienen como objetivo sensibilizar más al personal y qué actitudes tomar para evitarlas así como valorar su percepción

también vamos a impulsar los órganos de consulta y participación a nivel corporativo de los trabajadores y sus representantes en materia de prevención de riesgos laborales vamos a incluir de forma específica los aspectos relacionados en el trabajo vamos a poner también en marcha una nueva campaña de sensibilización entre los trabajadores sobre el problema de las situaciones de violencia de forma que impulsemos

mejora del registro y homogeneización de lo que registramos por su parte a la hora de abordarlas porque el registro

verá que hay unas diferencias enormes de centro y territorio y probablemente somos una sociedad más homogénea en estas actitudes que lo que el registro demuestra vamos también a incluir en el plan de formación global de osakidetza nuevas acciones formativas

con la violencia externa contra profesionales sanitarios y vamos a seguir apoyando legalmente desde la asesoría jurídica a todos aquellos que lo necesiten vamos a seguir formando a nuestro personal para mejorar su seguridad vamos a seguir investigando todas

de las que tengamos constancia vamos a seguir impulsando comisiones específicas y vamos a seguir mejorando nuestras instalaciones es decir vamos a intentar

la idea central de la campaña de sensibilización que en su día hicimos y que hoy sigue teniendo su valor aquella campaña tenía como lema gracias

zure begiruneagatik y buscaba poner en valor la importancia y necesidad del respeto compartido entre el personal sanitario y la sociedad a la que sirve para generar un entorno de respeto y convivencia adecuado para todos es fundamental que interioricemos que el respeto entre los profesionales y la sociedad a la que sirven

lópez de munai jauna zurea da hitza el pasado dieciocho de febrero en la comisión de salud
y consumo el consejero jon darpón y la directora de kontsumobide

manifestaron que el acuerdo logrado por eroski y las entidades financieras en relación con las aportaciones subordinadas no era el acuerdo que le hubiera gustado al gobierno sin embargo

más beneficioso para los y las afectadas que acudir a la vía judicial

datos que han sido contradecidos por las asociaciones de consumidores parecería que se les ha pedido como gobierno

el posible canje a nivel político y sean ustedes unos publicistas más de dicho canje en favor de las entidades financieras la función del gobierno hasta donde

sería cumplir con lo que aquí se aprobó el seis de junio y por otro lado dar cobertura a los y las afectadas y no a los bancos por todo ello le planteábamos la pregunta señor darpón y nos gustaría saber si avala políticamente usted que haya

en dicho canje poner en riesgo una vez más a los y las afectadas vendiéndoles o canjeando sus productos subordinados por más productos subordinados

no es el que hubiera satisfecho al gobierno hubiesemos deseado una solución mejor y más pronta para las personas afectadas señala usted que apoyamos el acuerdo y sus contenidos dando a entender que sería más beneficioso para los afectados que acudir a la vía judicial

han apoyado una y otra vía insisto ni una

en todo momento hemos defendido que el trabajo de kontsumobide ha posibilitado que eroski y las entidades financieras ofrezcan una propuesta a las personas afectadas lo que apoyamos y vamos a continuar apoyando es que las personas que adquirieron las afs de eroski tengan alternativas para intentar paliar el problema alternativas de elección voluntaria ez nik

parte de las asociaciones con lo cual por lo que parecería al menos y si ustedes no hacen una critica

en el mismo sentido en lo que se refiere al canje no solo al grupo de euskal herri bildu sino que al resto de los grupos también nos generó bastantes dudas de cuál era su postura en relación al canje o al posible canje más allá ustedes

ven como una solución pausible como una solución buena para los y las afectadas más allá de que haya alternativas diferentes que un producto subordinado

es una solución válida para ustedes poner en riesgo a la ciudadanía con productos financieros de alto riesgo sí o no porque ahora también habría que decir una cosa que en ese canje las personas

decir que no sabían qué estaban comprando fueron engañadas y las mismas personas que fueron engañadas ustedes les están diciendo que como alternativa van a salvar

o podrían llegar a tener un problema económico en el futuro porque son productos subordinados

les van a decir que quienes van a salvar la cara son las entidades financieras y van a salvar la cara porque parece que aquí la responsabilidad

y penal que deberían tener esas entidades financieras y los y las responsables de esa gran estafa en la venta no tienen ningún tipo de responsabilidad porque con ese canje lo que se hace es lavar la cara y políticamente esa es responsabilidad suya también

en ningún momento se está poniendo o no lo he hecho por ahora el trabajo de kontsumobide en ningún momento y no me parece mal que se busquen alternativas nada mal lo que le estoy pidiendo a usted es que diga claramente a favor o en contra de que entre esas alternativas haya productos financieros de alto riesgo nada más

en la comparecencia de la comisión y usted estaba presente yo dije textualmente se lo voy a volver a leer nosotros hemos trabajado desde el inicio con todas las partes para aproximarnos el máximo posible para que fuera devuelto el cien por ciento pero esta es la solución que hemos podido alcanzar con las partes implicadas es una opción más que las que había hace unos meses y no obliga a nadie es a día de hoy la única alternativa que se ha puesto sobre la mesa frente a la vía judicial o mantenerse en la posición

previamente tenía y aquí finalizo la cita pregunta usted si el gobierno garantiza productos subordinados de alto riesgo mire ni este consejero ni el gobierno garantizan ni apoyan productos subordinados este gobierno ni ha emitido los productos subordinados ni los ha comercializado

y no tiene capacidad para invalidar estor productos subordinados y devolver lo invertido a los afectados

sentimos profundamente la situación a la que se enfrentan muchas de estas personas desde kontsumobide desde el departamento de salud y desde el gobierno estamos intentando defender y defendiendo a las personas consumidoras no estamos haciendo mediación en esta ocasión la mediación hasido una mera herramienta para intentar aportar una solución que previamente no había

les garantizo que lo que realmente nos hubiera gustado sería que las partes hubieran propuesto un acuerdo para abonar el cien por ciento del capital de las aportaciones a todas las personas pero tengan ustedes claro que en las circunstancias actuales las partes implicadas

no han permitido ofrecer una solución por un importe superior a la alternativa propuesta ni han ofrecido un bono que no sea subordinado que se pidió desde kontsumobide finalizo con la cita textual también que dije en la comisión ni el departamento de salud ni kontsumobide

lo que en su día dijimos y no tenemos ningún problema en repetirlo es que estamos satisfechos de haber sido capaces de poner una opción más sobre la mesa nada más

pero es una opción más que las que había hace unos meses y no obliga a nadie llega mi cita de la comisión sinceramente y para finalizar me pregunto si lo que está ocurriendo con las sentencias los autos aclaratorios y los recursos ya planteados no invita a pensar que la propuesta tras la de kontsumobide no sea más que una opción más

fue multado por un inspector de euskotren en el tranvía de vitoria gasteiz por no disponer de billete y expulsado del convoy una vez llegado a la última parada

fue su esposa la encargada de pagar el billete de ambos con la tarjeta

y la guardó en su monedero porque según dice su marido no puede llevar nada encima porque el alzhéimer le hace no saber para qué sirven las cosas

que impidió que el afectado pudiera salir de él quedándose solo en su interior al encontrarse aturdido y desorientado permaneció en el tranvía hasta su última parada donde un inspector de euskotren le instó a bajar

a pesar de las explicaciones dadas por el jubilado y las evidencias de su estado de confusión y aturdimiento el inspector procedió a imponerle una sanción de veintiuno coma treinta y cinco euros por no llevar el billete consigo y abandonarle a su suerte en la parada de ibaiondo afortunadamente el incidente no llegó a mayores

y señora consejera digo afortunadamente porque tanto usted como yo sabemos que en los medios de comunicación han salido casos donde personas con esta tipología de enfermedades que han desaparecido desgraciadamente no han tenido este final señora consejera cerca de tres semanas ha necesitado euskotren para reunirse con la familia

para pedirles disculpas por el incidente y retirarle la sanción euskotren ha necesitado la denuncia pública en los medios de comunicación de lo sucedido euskotren ha necesitado que el pasado veintisiete de febrero este parlamentario registrara esta pregunta oral

ha sido el pasado miércoles cuando el señor ugalde director adjunto de euskotren se reunió con la familia para disculparse por el trato

en la que sencillamente se indicaba el motivo de la sanción de los veintiuno coma treinta y cinco euros

de la persona enferma de la cuantía en metálico ya que habían tenido que desembolsar el importe

nuestra obligación es que esos servicios sean de calidad pero también humanos señora consejera estoy totalmente convencido que si hubiera sido su familiar o del señor palomino director

el mío o de cualquier miembro de esta cámara hubiéramos actuado igual que esta familia parece ser que el señor ugalde ya en dicha reunión reconoció

no queremos utilizarlo como arma política contra el gobierno porque este incidente también podría haber sucedido durante el gobierno del lehendakari lópez y del consejero arriola simplemente queremos preguntar qué medidas va a adoptar euskotren para que este tipo de incidentes no vuelva a suceder si han decidido dar algún tipo de formación especial

y si van a establecer algún tipo de protocolo de actuación con las personas que presentan síntomas

nos ha hecho usted un relato novelado

pero que obedece a lo que apareció en un medio de comunicación efectivamente usted ha traído ese relato aquí sin contrastar exclusivamente el del medio de comunicación

yo le voy a contar lo que ocurrió lo que ocurrió después de haber hablado

que estaba ese día trabajando en ese tranvía y también de un agente de seguridad de un vigilante de seguridad que

y con los que hemos hablado de manera independiente y nos han dado la misma versión de los hechos

efectivamente sobre la una y media a la altura de la parada de landaberde el agente antifraude se dirigió a un viajero de unos setenta años

el señor indicó al antifraude que su esposa se había bajado en la parada anterior y que ella tenía el título del viaje al no poder comprobar este dato

como el viajero no tenía más que veinte euros el agente abonó la diferencia de su propio bolsillo para poder zanjar el asunto con los veinte euros al finalizar el trayecto en ibaiondo

al viajero que si presentaba la tarjeta validada como el decía que había ocurrido que la validación se había hecho que la presentase en la oficina de información del tranvía de la calle sancho el sabio y que se le devolvería el dinero los veinte euros que había abonado

que se había pasado de parada le indicaron que podía volver a coger el tranvía

aquello de abandonado a su suerte y todo eso pues no por supuesto podía utilizar el tranvía sin tener que adquirir billete para volver a la parada de la que se había despistado porque iba hablando con los agentes de euskotren pero el señor les respondió que él vivía en landaberde y que volvería andando a su casa

el viajero no presentaba ningún problema físico ni mental aparente y actuaba con total normalidad

por todas las partes y en ningún caso se observó discusión alguna esto fue lo que ocurrió en el tranvía pero efectivamente

pues nos preocupa nos preocupa que ocurran estas cosas porque nosotros queremos dar servicio a la ciudadanía y un servicio lo más humano posible efectivamente la carta que se le envía al día siguiente

es una carta modelo digamos donde se le dice que ha ocurrido esto

pero visto lo ocurrido qué hemos hecho a partir de ahí pues

nos hemos puesto en contacto con la asociación de familiares de personas de alzhéimer de araba porque nos hemos dado cuenta de que es una enfermedad que puede no mostrar en un momento dado signos externos y puede llevarnos a este tipo de situaciones

nos ha mostrado su interés para colaborar con nosotros en mejorar las formas de actuación y en mejorar la formación y en incluir dentro de los planes de formación de los agentes de euskotren

que vamos a trabajar con ellos y que vamos a incorporar le diré para su tranquilidad y esa es la verdadera historia de este tema más allá de la página tres de el correo

sí señora presidenta con su permiso desde el escaño lamento que el debate lo que se centre es

y es lamentable que la consejera simplemente tenga en cuenta lo que digan los trabajadores de euskotren y no crea

y simplemente dar las gracias a la señora consejera por su respuesta y espero que las medidas planteadas que nos ha trasladado sean efectivas para que incidentes de este tipo no vuelvan a pasar en un servicio público como es euskotren muchas gracias

hartutako akordioari buruz prieto jauna zurea da hitza sí presidenta señorías consejera hace unos días se hizo público un acuerdo

la sociedad de promoción del aeropuerto de vitoria en la que se programaba una serie de vuelos con nueva york

que se hizo según la información que dispongo por unanimidad y en la que se planteaba como he dicho una serie de vuelos quisiéramos saber a este respecto qué vuelos van a ser cómo se van a hacer

cuál es la aportación del gobierno qué retorno tendrá qué se espera con este tipo de vuelos de cara al futuro y lo queremos saber además en un día en el que contrariamente a lo que para el alcalde de vitoria el otro día fue un sorpresón

en el debate del estado de la nación hoy se anuncia que del hmenos veinticuatro de las veinticuatro horas abierto el aeropuerto nada

se vuelve a dar una vuelta de tuerca en esta situación precaria de este aeropuerto y por lo tanto sería bueno también saber en relación con este objetivo que tiene el gobierno con estos vuelos

de esta nueva vuelta de tuerca porque aparentemente cuando se está intentando hacer un esfuerzo para conseguir que tenga más

actuaciones el aeropuerto de vitoria a pesar de ese acuerdo que se suscribió con ustedes en madrid

es que este aeropuerto va a seguir teniendo dificultades operativas esto es lo que queremos conocer

una vez más volvemos con el aeropuerto de foronda efectivamente el consejo de administración de la sociedad de promoción del aeropuerto

el veinte de febrero aprobó la puesta en marcha de una operación que consiste en fletar y comercializar dos vuelos

algún sitio se ha querido hacer ver o parecer hacer ver

dos vuelos ida y vuelta foronda nueva york en el mes de septiembre

ver cómo se desarrolla todo eso me pide usted nuestra valoración desde el gobierno vasco como he dicho antes también en una anterior pregunta valoramos también esta operación

que usted como bien sabe son entre otros objetivos

en ese modelo de un aeropuerto con tres terminales y por supuesto también trabajamos en incrementar las oras en que el aeropuerto esté abierto hasta conseguir su plena

señora consejera si el aeropuerto de foronda no nos sirve para hacer vuelos

y por eso tendremos que seguir hablando del aeropuerto de foronda

que en realidad no es nada más que un brindis al sol

no tiene esa capacidad operativa hoy usted además nos precisa una noticia que yo creo que en la opinión pública y en la opinión publicada estaba con otra dimensión se habían hablado de cuatro vuelos ahora resulta que es uno ida y vuelta bueno uno ida y vuelta o dos ida y vuelta pero al final

en este momento en el que de nuevo y pese a ese sorpresón de hace unos días el aeropuerto va a seguir cerrado que además pesa una amenaza

cerrar los sábados y domingos por tanto de tener menos operatividad cuando de la que participa el gobierno vasco hace este acuerdo este acuerdo por unanimidad lo hará porque esto le da alguna dimensión le da alguna entidad le da

y para eso puesto que se ha hecho un acuerdo queremos saber este acuerdo qué alcance tiene

o sino le cuesta nada si va a retornar el dinero que tenga que invertir si ya hay un operador que vaya a trabajar con él

tanto anuncio para que al final no haya ninguna sustancia o usted no nos pueda informar de nada qué acuerdo es el que ha tomado cuáles son los aspectos concretos del acuerdo

no nos contestará pero entonces yo le volveré a preguntar y en esta ocasión pues ya se lo preguntaré por escrito y ya se lo preguntaré con todo lujo de detalles si se niega a contestar

este es un acto de control parlamentario es una pregunta muy concreta usted ha hecho un acuerdo no creo que le tenga que costar tanto

o es que no sabe que acuerdo ha hecho eskerri asko prieto jauna erantzuteko oregi andreak dauka hitza

señor prieto usted ha hecho un acuerdo yo no he hecho un acuerdo

nosotros hemos tomado parte en ese acuerdo yo no he hecho un acuerdo usted tanto anunció yo no he hecho tanto anuncio no sé quién ha hecho anuncio porque yo

son dos vuelos de ida y vuelta dos dos rotaciones y el acuerdo es para trabajar en eso la operación está establecida de esta manera un coste de contratación aproximado de quinientos mil euros aproximado porque todavía no está definido se está definiendo el acuerdo es para que se defina

es decir gobierno vasco diputación foral de araba y ayuntamiento de gasteiz además de la cámara de comercio de araba los ingresos de la operación se obtendrán por la comercialización de las aproximadamente quinientos plazas por cada una de las dos rotaciones

no se trata de una subvención nunca nos hemos manifestado de acuerdo con subvencionar vuelos que luego tienen el desarrollo que todos conocemos por tanto en este caso no se trata de una subvención a una compañía aérea ya que via actuaría como comercializador beneficiándose de los ingresos por venta de billetes